cuatro punto uno cuatro punto dos cuatro punto tres cuatro punto cuatro cuatro punto cinco cuatro punto siete cuatro punto ocho cuatro punto nueve cuatro punto diez cuatro punto once

cuatro punto veinticuatro cuatro punto veinticinco cuatro punto veintiséis cuatro punto veintisiete

cinco punto uno cinco punto dos cinco punto tres cinco punto cuatro seis punto uno seis punto dos seis punto tres siete punto uno siete punto seis siete punto siete ocho nueve punto dos nueve punto tres nueve punto cuatro nueve punto seis y nueve punto siete horiek denak

tres catorce cuatro trece cuatro diecisiete cuatro veintiocho aldeko botoak

y once aldeko botoak

la transaccional entre la cuatro de upyd y la veintitrés de euzko

y cuál es el resultado berriro bozkatuko dugu transakzionalaren

orain beste transakzional bat otra transaccional entre la nueve de upyd y doce de euzko abertzaleak hamabi eta